subrayar la importancia que tienen los medios de comunicación en la transmisión de la cultura y de la lengua de un país esto que digo podría parecer

bermatu beharko lukeen helburua hau da euskara sustatzea y como decía si bien es distinta la realidad de los canales televisivos concretamente en e i te be

para garantizar el cumplimiento de su misión del servicio público en lo que se refiere al fomento al euskera hay que tener en cuenta que las horas de emisión y lo hemos dicho aquí más de una vez no son un indicador valido

una y otra vez en esta cámara un cero técnico de audiencia algo que por desgracia ocurre durante muchas de las horas de emisión de e te be uno

todo ello no suma nada en favor del euskera horrek

de esta misión de servicio público de etb etb tiene que garantizar la dimensión formativa y educativa de su programación

no hace de forma suficiente proposamen bat helarazi dizuet hau da

antenan egon den serierik urtetsuena y en lo relacionado con la enseñanza del euskera

programa dedicado a la enseñanza del mismo formato del mismo a la enseñanza del euskera en formato televisivo por supuesto

hoy en día no tendría cabida en la euskal telebista

que un programa de esas características igual hoy en día no funcionaria pero nuestra reflexión debe ir dirigida a qué tipo de programa

antzematen ditugu argi eta garbi ser audaces a la hora de diseñar la programación no es incompatible

ni con el objetivo educativo mencionado es más debería ser una condición de cualquier medio público de comunicación orientado a la formación cultural de la ciudadanía algo que no es incompatible

vinculados con el ocio como los programas musicales o los relacionados con realidades cercanas a las audiencias jóvenes noski

parlamentarias señora consejera señor lehendakari quiero empezar esta intervención hablando en un correcto español aunque parezca un contrasentido que sea precisamente la representante de euskal herria bildu pues la que

pues hable en castellano pero no se me ha ocurrido otra forma mejor de expresar el contrasentido que supone también que una radio televisión pública vasca que se creó para el fomento del euskera y la cultura vasca pues destine la mayor parte de sus esfuerzos en promocionar y en impulsar

la preocupación y reflexión que hoy tratamos en el pleno y nuestras propuestas las diferentes propuestas ya las incluimos también

de propuesta de reforma de e i te be las socialistas vascas lo hicimos público he hablado de ello en reiteradas ocasiones entonces

que los datos socio lingüísticos con una evolución ascendente y positiva en el conocimiento comprensión del euskera era exactamente la inversa a la que se daba en la audiencia de los canales televisivos exclusivamente en lengua vasca y lo decíamos creo que de manera literal y creemos y entendemos que en la actualidad ese problema y esa preocupación persiste

obviamente y buscar las soluciones a un hecho que es evidente y que todos y todas conocemos que ofreciendo programas en euskera en e i te be luego estos no son respaldados por la audiencia aquí podemos insistir en discursos más o menos grandilocuentes afirmando todos todas

ser una oferta diferenciada podemos hacerlo podemos seguir haciéndolo debemos hacerlo pero si la audiencia no acompaña si la audiencia no acompaña

destinado y que se incrementa además anualmente no podemos seguir en la misma situación haciendo los mismos programas que no son respaldados por la audiencia

que afecta al conocimiento del euskera al problema que hablaban en concreto en la parte dispositiva de su proposición no de ley el grupo proponente elkarrekin podemos pero que afecta de manera mucho global a lo que se decía en su justificación de la proposición no de ley que hablaba de la función de la labor de fomento del euskera y de la cultura vasca

creemos que precisamente con eso está relacionado y por eso por esa es la razón por la que entendíamos que al margen

que se puedan hacer actuaciones concretas en la programación es un debate que debe de afectar debe de ser incluido

integral a la vez que se hacen actuaciones concretas como se ha plasmado además en la enmienda transaccional que ha sido

por el partido nacionalista vasco eh bildu y el grupo socialista porque si el principal objetivo de e i te be

los canales de televisión de e i te be también de e te be uno y de la radios

es ser un mejor servicio público cosa que estamos intentando hacer debatir y lograr en esa ponencia si ese es su objetivo

siendo respaldado por la mayoría de la ciudadanía vasca que no puede hacerlo de otra manera que es dándole audiencia por tanto si mejoramos ese servicio público

y de la cultura de nuestro país lo haremos siempre muchísimo mejor

servicio público que pagamos todos los vascos y vascas además a través de los presupuestos es respaldado por la audiencia siguen

o de otra por parte de las personas que me han precedido en el uso de la palabra de las portavoces y se dirá también más adelante

varias y pueden ser múltiples en concreto de la falta de respaldo de e te be uno cuestión que no sucede por ejemplo

que tienen un funcionamiento diferente pero también es cierto que hay algunas de las ofertas de programas

contados pero han funcionado también en e te be uno sin embargo nosotros entendemos que la responsabilidad de un parlamento y de unas fuerzas

no es diseñar la programación de e i te be o hacer los programas de e i te be nosotros entendemos que podemos pronunciarnos podemos consensuar

cómo debe ser esa e i te be y cómo debe de cumplir esas funciones del servicio público

en esta proposición no de ley pero programadores programadores de televisión yo mejor una vez aclaremos

de la mejora del servicio público y cómo cumplir mejor sus funciones lo hagan los y las profesionales del ente las personas que están capacitadas para realizar esa programación no sé si a mí me parece que es el parlamento lugar adecuado para hacer programas o para decir cuánta

a una cosa u a otra para eso creo que sinceramente no están

estemos muchas de las personas presentes aquí capacitadas yo no

por eso decíamos que aunque compartimos

de la proposición no de ley se nos quedaba corta la propuesta

entendíamos que podía hacerse una actuación mucho más amplia que sirviera en esa reforma integral que nosotros entendemos necesaria para que mejore la radio y televisión pública vasca como servicio público y por lo tanto cumpliendo esos objetivos que están en la ley y entre ellos el fomento del euskera y de la cultura del país y también a la vez por qué no también se pueden realizar actuaciones particulares y concretas algunas de esas las hemos intentado plasmar

transaccional porque eso es verdad que a lo mejor no está

el grupo proponente pero se ha intentado incluir o en el ánimo

transaccionado estaba incluirla igual que se puede hacer otras actuaciones concretas como

cambió lo citado en varias ocasiones el partido de pelota y se puso el campeonato

que pueden aupar y empujar a la cadena a lo que se dice siempre porque lo he oído yo creo en palabras de todos los grupos parlamentarios debe ser el buque insignia de e i te be que es e te be uno se puede hacer eso se puede optar también por ejemplo por dar la cobertura a asuntos de gran demanda informativa

o todo lo acontecido entorno a cataluña podía haberse hecho en euskera nosotros entendemos que cuando más demanda información

más demanda información por ejemplo en esos acontecimientos extraordinarios el que sea en euskera pues también son decisiones puntuales que puede ser un programa puede ser la cobertura

o puede ser las que he citado antes de cambiar en un momento dado la programación de la pelota por el campeonato

eso es función de un parlamento yo creo que la función del parlamento es procurar una reforma y procurar también a través de la comisión de control una supervisión adecuada

del euskera y de la cultura vasca y a través de eso intentar que se cumplan pero hacer programas creo que no va a ser suficiente para lograr

y francamente no sé si estamos capacitados para hacerlo no les voy a decir ya lo que considero

cómo hacer un programa en la radio y televisión

pública porque hay también otras y privadas esa era la voluntad simplemente de no haber apoyado esa propuesta y haber hecho una propuesta mucho más integral en la que de verdad al menos digo por mi parte intentábamos tomar también las aportaciones del grupo de eh bildu concretas y también la del grupo

gracias señora presidenta buenas tardes a todos bien yo creo que la primera cuestión

se ha mencionado hoy aquí y se ha mencionado en otras ocasiones es si

de la ponencia ya impide o es incompatible con el debate de este tipo de propuestas nosotros entendemos desde nuestro grupo

queremos señalar que evidentemente la existencia de una ponencia sobre la reforma integral de e i te be sí influye sobre algunas de las propuestas a debatir y a plantear en este pleno por ejemplo se han planteado iniciativas de reformas de la ley de creación del ente referidas a

propiamente ha considerado que no debieran de plantearse porque existe una ponencia precisamente para esa reforma integral de e i te be y que por lo tanto de haberse aprobado nos encontraríamos con dos ponencias una que

por lo tanto cuando esas propuestas que se hagan sean transversales que supongan modificaciones generales

sí creemos que su debate o su puesta en marcha pudiera chocar con la ponencia

pero existen otras iniciativas como la que hoy ha traído aquí el grupo podemos mucho más concretas mucho más específicas cuyo planteamiento es perfectamente a nuestro juicio compatible con la existencia de una ponencia porque creemos que esa existencia la existencia de esa ponencia

un instrumento para cortar debates para impedir debates porque eso nos podría llevar a la tentación de que cuando uno no quiere debatir sobre

esos temas desaparecen de este pleno nosotros consideramos que el máximo órgano de debate y decisión en euskadi es este el pleno de esta cámara y creemos que no se pueden hurtar debates ni transparencias a este pleno

hay temas que en sí mismo tienen que ver con el objeto de la ponencia con la reforma integral de e i te be y que por supuesto debiera ser reconducidos allí

y esta es un ejemplo de ellas que son mucho más puntuales que simplemente lo que vienen a nuestro juicio a enriquecer esa labor de e i te be pueden perfectamente plantearse debatirse y votarse sin que ello influya ni a la existencia

de la propia ponencia en segundo lugar voy a pasar a hablar de la propia propuesta en sí tal y como se señala en la iniciativa los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la transmisión de una cultura y de una lengua propia es más ese

que presentaba inicialmente el partido nacionalista vasco y el partido socialista se planteaba que tendríamos que ver cuál es el papel de e i te be en la transmisión de la cultura vasca y del euskera no hay que planteárselo como bien se ha dicho aquí

programa firmado por el ente y el gobierno vasco como en el plan estratégico de e i te be como servicio público que son nuestra radio y televisión pública deben de cumplir una misión en impulsar el uso del euskera es más el contrato programa dos mil dieciséis dos mil diecinueve que define los contenidos de la misión de servicio público asignado a e i te be fija la descripción del servicio público que ofrece e i te be los compromisos que asume para su prestación actividades y objetivos y sociedades estableciendo la contraprestación del gobierno vasco

a cumplir a e i te be promoverá según este contrato la difusión de contenidos creaciones y actividades elaboradas y desarrolladas en euskera en los distintos ámbitos sociales reflejará en sus emisiones la realidad social bilingüe y fomentará la puesta en valor del bilingüismo como un elemento social de equidad cohesión y modernidad

en una de sus líneas estratégicas concretamente en la tres se proponía reforzar la audiencia en euskera de e i te be y para ello expresamente se dice que buscará activamente el encuentro

de esta manera e i te be es un instrumento capital para afianzar tanto

cumpliendo así la misión fundamental encomendada por la ley de creación

el papel que e i te be debe de tener en la enseñanza conocimiento y difusión del euskera ya está claro ya está recogido tanto en la propia ley de creación del ente como en el plan estratégico

que hagan efectivo el cumplimiento de ese papel efectivamente como se ha dicho aquí acciones del dos mil dieciocho y adaptadas al dos mil dieciocho nuestro grupo siempre ha defendido la importancia de e i te be como medio en euskera como misión de difundir el euskera

de informar en euskera es cierto que tal y como dice la iniciativa medios como la radio en euskera es cada vez más escuchada por más jóvenes en un contexto en el que cada vez más jóvenes son euskaldunes sin embargo esto no sucede así con la televisión

por ser el vehículo más importante en euskera sin embargo

tiene una audiencia muy baja que no ha llegado el año pasado al dos por ciento por ejemplo recientemente lunes

uno coma tres por ciento el domingo ocho llegó al cuatro por ciento pero saben por qué por meza santua por la santa misa que es la consiguió un trece coma seis por ciento y un veintinueve coma dos entre los euskaldunes que uno de los programas más visto en la e te be uno sea la santa misa y se lo dice una persona que es católica

uno coma seis por ciento y durante la tarde cero técnico cuando se dio cuenta en esta cámara del cumplimiento de esta misión se puso de manifiesto

que este era el indicador empleado pero creemos que esta medición no es ni correcta ni suficiente no se puede decir que se ha cumplido un objetivo simplemente teniendo en cuenta las horas emitidas sin ningún tipo de criterio más nosotros hemos señalado en muchas ocasiones que las audiencias tampoco pueden ser el único indicador a tener en cuenta que el carácter de servicio público del ente tiene que ser considerado pero es evidente que un reflejo del interés de la ciudadanía de que es una televisión atractiva

del euskera es la audiencia es un indicativo en un momento en que la sociedad es cada vez más euskaldun sin embargo vemos que hay un menor interés de esta sociedad de ver la tele en euskera es verdad y

de acceder a los medios de comunicación pero también es cierto que hay que ofrecer programas atractivos programas propios que puedan atraer al público euskaldun programas como digo con formatos atractivos cercanos a la realidad de los jóvenes y yo creo que no podemos decir desde esta cámara

pero sí inspirar o decir qué programas a nuestro juicio debieran ser emitidos en el año dos mil diez

en el año dos mil diez un parlamentario que hoy está en esta cámara que en ese momento estaba en la oposición decía a propósito de la dirección de e i te be

que la cadena requería fortalecer su programación tanto entretenimiento como de información sigo textualmente decía ahora en el consejo de administración se nos entrega un informe para impulsar una reflexión sobre el futuro de e te be uno

en el que no se ha relanzado la cadena todo lo contrario ha ido perdiendo audiencia mes a mes

el problema es que el centro de producción de programas miramón está vacío de contenidos esto se decía en el año dos mil diez ahora ese parlamentario está en uno de los grupos que apoya al gobierno pero las palabras que él decía se pueden aplicar a esta dirección perfectamente y esta dirección no lleva un año como cuando habló aquel parlamentario no lleva más de cinco y lejos

ha empeorado con relación al dos mil diez por eso creemos que es hora de pasar a los hechos y creemos que propuestas concretas como la que ha traído hoy aquí el grupo elkarrekin podemos puede ser perfectamente puede ser objeto de debate

vamos a apoyar la iniciativa original por eso nosotros no presentamos enmienda no va a salir también apoyaremos la enmienda de transacción porque en cualquier caso

mejor es algo que nada y lo plantearemos en la ponencia nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea erantzunen txandara pasatuz

las cosas no siempre se crea y además esta ponencia está creada a propuesta del partido popular la de reforma integral por lo tanto no siempre

parcialmente se puede trabajar en este parlamento no haciendo mi opinión programas porque no es nuestra labor ni mandar lo que se debe hacer sino mejorar nuestra televisión y radio pública como servicio público que es y hacerlo de manera mucho más global en la ponencia

no había acusado en absoluto eso evidentemente la necesidad de la ponencia para reforma integral de e i te be

está clara de hecho nosotros propusimos la creación de esa ponencia pero de lo que yo no he dicho de retrasar de lo que he dicho es que lo que no se puede es utilizar

o para no debatir determinados asuntos en el pleno creo que es verdad que hay temas y nosotros mismos lo hemos dicho deben ser reconducidos a la ponencia

que son perfectamente como digo susceptibles de votación

gracias señora presidenta buenas tardes de nuevo a todos lehendakari bueno no prometo ser breve porque seguro que no lo voy a ser y luego

interpelaba a la señora tapia en esta cámara a propósito de la línea cuatro del metro de bilbao y quiero empezar

este gobierno sobre todo el partido nacionalista vasco en este gobierno y en el anterior

qué se ve aquí qué ven ustedes aquí personas vecinos de los barrios de rekalde

porque la línea cuatro afecta a eso a personas concretamente a setenta mil vecinos vecinos a quienes

de manera reiterada una infraestructura que nunca llega que nunca parece ser prioritaria el pnv

este gobierno ha hablado mucho de escuchar a la ciudadanía pues bueno habrá que preguntarles si durante todo este tiempo de verdad ha escuchado a la ciudadanía

o si como ellos se consideran son unos vecinos de segunda que se les puede dejar esperando y esperando siempre porque llevan diez años

en la interpelación pero es importante repetirlo para que vean la paciencia que han tenido estos vecinos desde que se les prometió que la línea iba a existir porque en enero del dos mil ocho fue cuando se hizo público el trazado de la línea cuatro

atendiendo a las exigencias vecinales que lo que exigían es que la línea tres

junio de dos mil nueve se suprime la línea de tranvía que estaba proyectada para que llegase a rekalde y ya se empieza a estudiar esta futura línea

afirmó que las obras comenzarían a finales del dos mil doce y el señor arriola que su apertura estaría para el dos mil dieciséis y anuncian que las cocheras se iban a ubicar en rekalde año dos mil once se aprueba el anteproyecto de la nueva línea y se pone de manifiesto que la ejecución duraría cuarenta y siete meses finales del año dos mil catorce

se dice que los vecinos de rekalde no son una prioridad y voy a volver a citar a la señora oregi como hice en la interpelación que siendo la consejera del ramo dijo que ni del dos mil quince había partida pero que tampoco la iba a haber ni en el dos mil dieciséis ni en el dos mil diecisiete porque había otros proyectos

septiembre de dos mil quince desde la diputación foral de bizkaia por boca del señor reyes consejero de transportes cuando se le pregunta por esta infraestructura por parte de nuestro portavoz en juntas generales

y que la redacción del proyecto constructivo de esta línea correspondiente al tramo de moyua se licitaría en noviembre de ese año pero lástima que la voluntad del señor reyes no vino acompañada de hechos y esto no se hizo quizás no sé si para la diputación

desde luego para el gobierno parece que no son una prioridad febrero del año pasado portavoces del departamento competente en infraestructuras vuelven a reiterar

y anuncian que hasta el dos mil veinte salvo trámites administrativos nada eso sí los grupos que apoyan al gobierno presentan una enmienda

que nos alegramos enormemente pero presentan una enmienda hablando ya del dos mil diecinueve igual porque es campaña electoral el dos mil diecinueve

seguro que no igual algunos vecinos lo piensan porque saben lo que suelen decir los vecinos de rekalde

porque aparece y desaparece aparece en campaña electoral y desaparece en los periodos inter campañas

nacionalista vasco tiran de esta línea también de la línea cinco de galdakao y entonces aparece la apuesta por las líneas de metro el compromiso por la sostenibilidad se lleva en los programas electorales se recogen en los acuerdos pero luego no acaban de ver la luz también el partido socialista en el año dos mil catorce

decía que los socialistas volverán a pedir la línea cuatro del metro que sea una realidad para unir rekalde con el metro de la ciudad y se apostó por el crecimiento futuro de bilbao centrado en los barrios altos y nosotros estamos de acuerdo absolutamente con estas palabras

no se sienten los protagonistas lo que se sienten es los olvidados

olvidados porque cuando llega la hora del compromiso político y económico se sienten que son siempre los últimos de la cola

la apuesta por esa línea la apuesta por este barrio de bilbao esa apuesta se queda en puro eslogan y no se lo merecen no puede ser un recurso electoral los vecinos de rekalde no pueden quedarse reducidos a un recurso electoral a una promesa electoral

hora de tomar acciones ya es hora de que los compromisos vayan más allá de la planificación y de la reflexión que es hora de acciones que supongan

en las que se plasmen esa apuesta por la sostenibilidad debemos se deben de tomar decisiones

es una prioridad y acompañarlo ello con medios presupuestarios lo hemos dicho en otras ocasiones cuando se reclama por parte del partido nacionalista vasco o por parte del gobierno vasco infraestructuras a madrid poco han importado que se tratase de ejercicios en los que había dificultades económicas

si no se reflejaban en partidas esos compromisos se decían que no existían se decía que euskadi no era una prioridad

de estrecheces presupuestarias el gobierno de españa siempre ha apostado por euskadi pues bien es necesario que el gobierno vasco

esta línea se hace a medias también se comprometa con bilbao con el barrio de rekalde porque no es posible estar pensando siempre

continuo de qué infraestructuras de transporte son las más adecuadas cuáles son las más eficientes para dar el mejor servicio posible porque entonces no vamos a llegar nunca

analizar cómo estaba el transporte en su conjunto y me acusó de que es que a mí no me gustaba la autoridad de la movilidad y no se trata de que me guste o no me guste es que no se trata de eso de lo que se trata es de que no se utilice la autoridad de la movilidad

en la enmienda presentada inicialmente se hablaba de ella luego ya en la enmienda de transacción desaparece la verdad es que nosotros no tenemos un mayor problema con la autoridad

de la movilidad desaparecía ese planteamiento que se tenía que hacer en bizkaia que quien lo hace es la autoridad

para dilatar como elemento de retraso porque a este grupo lo que nos parece como

creamos la autoridad de la movilidad y nos vamos replanteando todo y mientras tanto pues va pasando el tiempo y en junio del año pasado

obtendría esa fotografía actual del sector y en el que se determinarían esas líneas maestras de las instrucciones para la siguiente década estos pliegos se aprobaron

del año pasado y por ejemplo una de las líneas que se planteaban que tenía que fijarse en el plan

más líneas de metro o no cuál es la conclusión

autoridad de la movilidad vuelva a decidir si la línea cuatro se tiene que construir o no pues

porque en el punto de partida al menos teníamos claro que la línea cuatro era necesaria ahora tenemos que esperar

que es necesario creemos que la línea cuatro es necesaria es algo que se decidió hace tiempo y que sigue

vigente y que lo que no se puede hacer es dilatar más el adoptar compromisos con esta línea de metro porque como decía hace ya diez años se veía la necesidad de esta línea los vecinos y las instituciones la necesidad de esta línea es cierto que ahora se dice que se van a plantear otras alternativas al transporte precisamente para quitar coches de las carreteras pero esas alternativas tienen que ser atractivas

y evidentemente el metro que no solamente conecta

que vertebra absolutamente la ciudad y el territorio histórico es uno de los medios más atractivos y que conseguirán de verdad hacer un transporte sostenible una ciudad sostenible que quite coches de la misma nosotros como digo

que presentamos a los presupuestos de este año enmienda que sabíamos que no era suficiente pero que lo que pretendía fundamentalmente era colocar en la agenda del gobierno vasco la apuesta por esta

metro nosotros lo que pedíamos era un compromiso y la verdad es que tenemos que alegrarnos tenemos que alegrarnos de la enmienda a la que hemos llegado porque esa enmienda que no se ha podido llegar en otras instituciones en las que

supone un avance y supone un compromiso un compromiso que esperamos que el gobierno cumpla supone un compromiso

para el año dos mil diecinueve en cuyos presupuestos habrá una partida económica suficiente para realizar el proyecto constructivo porque la verdad es que lo dije en la interpelación y lo quiero repetir aquí ahora creo que los vecinos de rekalde de lo que no se les podrá acusar

porque la verdad es que se conformaban exclusivamente con lo que nosotros presentábamos con que se hiciera el proyecto constructivo en un primer momento planteaban que se hiciera un cronograma que se dijera cuándo se iban a iniciar las obras cuándo se iban a acabar

ese mínimo compromiso de que el proyecto constructivo del tramo moyua rekalde se realice porque es verdad que el tramo matiko

en breve porque ya se ha licitado con lo cual yo creo que los vecinos de rekalde han sido absolutamente pacientes han sido absolutamente razonables porque están de acuerdo con lo que hoy vamos a aprobar aquí que desde luego se conforman con un compromiso que creo que no cuesta nada adoptar por eso yo como decía me alegro enormemente de que hayamos llegado a este acuerdo en el que instamos al gobierno vasco y al consorcio de transportes de bizkaia que a lo largo de dos mil dieciocho se

garantizando un proceso participativo que además yo creo que precisamente se hará y ya se está haciendo porque son vecinos muy comprometidos

han hablado creo que con todas las instituciones y en esa enmienda se recoge también que en el propio presupuesto del dos mil diecinueve haya una consignación económica suficiente

creo que hoy se está dando un paso adelante creo que este compromiso es bueno para

para los vecinos agradezco que hayamos podido llegar a este acuerdo y como decían los vecinos cuando les estuve acompañando línea cuatro de metro ya

nosotros siempre hemos concebido el metro en este caso cualquier infraestructura ferroviaria

de bilbao en este caso entendemos que supone un salto cualitativo en cuanto a la sostenibilidad en cuanto a la comunicación

ciudad y así lo hemos entendido y así lo hemos impulsado desde nuestras diferentes responsabilidades de gobierno entendemos

de bilbao puede ser un elemento que aporte y mucho a la cohesión social de la villa de bilbao porque al fin y al cabo va a permitir no solo un nuevo enlace un transporte mucho más cómodo mucho más sostenible mucho más accesible para los

de eso yo creo que ya va a permitir una mejor comunicación no solo de los barrios bilbaínos con el centro de la ciudad si no entre los propios barrios de bilbao entendemos que es un medio de comunicación claramente sostenible por tanto en cuanto a la sostenibilidad medioambiental también entendemos que es una firme apuesta una apuesta interesante y como decía es un transporte público que entendemos que es tremendamente accesible para todos los ciudadanos y ciudadanas además tiene mayores beneficios en la medida en que supone y así lo demuestran

en la propia ciudad de bilbao que así lo corroboran que destierran en importante medida el uso del vehículo privado y más allá de eso permiten incluso

urbanística de las ciudades por tanto nosotros los socialistas vascos siempre lo hemos tenido muy claro y hemos hecho una apuesta decidida por la extensión de líneas de metro a los diferentes

no iba a ser menos en cuanto a esta línea cuatro del metro que principalmente como decía es una apuesta vertebradora es un salto cualitativo en la movilidad de la ciudad

de rekalde nosotros entendemos que cuando un proyecto es de esta magnitud hay que creérselo y nosotros nos lo hemos creído y nosotros hemos intentado en la medida de lo posible

a dichos proyectos allá donde hemos estado hemos puesto toda nuestra voluntad siendo conscientes y también con responsabilidad que en algunos momentos

el impulso necesario por las circunstancias económicas pero siempre que ha sido posible nosotros hemos estado ahí para impulsarlo hoy el partido popular trae a colación esta cuestión y creo que debemos de partir de una base que es muy fundamental y creo que todos los grupos parlamentarios aquí presentes apuestan por esa línea cuatro del metro lo cual creo que ya es un punto de partida muy importante no les voy a ocultar

extrañeza esta propuesta en la medida en que el partido popular había incorporado o había presentado una enmienda a los presupuestos presupuestos que después se acordó con el gobierno con los dos partidos políticos que sustentamos el gobierno

bastante poco suficiente para poder impulsar un proyecto de esta magnitud en fin yo creo que se ha corregido de alguna manera mediante este acuerdo transaccional existirá una partida presupuestaria suficiente para poder

a determinadas actitudes o a determinadas maneras de gestionar que creo que no son

a destacar de este gobierno porque creo que tenemos que ser prudentes creo que tenemos que manejar datos concretos tenemos que saber de qué estamos hablando y a partir de ahí dar pasos por tanto creo

un tanto más prudente que la inicial y yo creo que redunda en positivo en la materialización de este proyecto y especialmente en la redacción

de bilbao en cuanto al proceso participativo que se proponía en la enmienda de

proyecto tiene las características la magnitud de esta proyecto y que además tiene unas afecciones muy claras

que un proceso participativo en el que los vecinos y vecinas puedan pronunciarse pues entendemos que también es una cuestión

oportunidad de participar e incluso tuvieron la opción de señalar cuáles eran sus preferencias a la hora de ubicar las diferentes estaciones qué quieren que les diga yo tengo la conciencia muy tranquila los socialistas vascos tenemos la conciencia muy tranquila porque precisamente fuimos nosotros allá por el año dos mil catorce quienes paralizamos el proyecto de tranvía

durante nuestra etapa en el gobierno fuimos nosotros quienes de alguna manera también entendimos que era la mejor manera de comunicar esos barrios de bilbao con el centro y con los diferentes barrios usted señora llanos comentaba que en fin que quizá

sea fruto de que estemos en las puertas de una campaña de municipales se lo he explicado anteriormente yo creo que no yo creo que es una cuestión de prudencia de ir paso a paso

y de consolidar un proyecto que entendemos que es de indudable relevancia para bilbao en definitiva en fin yo creo que

y en la agenda de este gobierno también porque está en nuestro propio acuerdo de gobierno el impulsar la construcción de esa línea cuatro de bilbao y no me cabe ninguna duda que a través de los presupuestos del año dos mil diecinueve y con la redacción

que esperemos y deseemos que teniendo siempre en cuenta la capacidad presupuestaria que tiene este gobierno pueda desarrollarse lo antes posible por tanto
esperemos que cuando llegue el momento de apoyar esos presupuestos tengamos el máximo apoyo por parte de todos los grupos parlamentarios eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

en primer lugar señora llanos he de reconocerle su persistencia con este tema

por año confesarle también ingenuo de mí que pensaba que tras llegar a un acuerdo su discurso iba a ser un poco menos ácido pero bueno ya nos conocemos y bueno por si acaso tenía también material preparado

dispositiva de su moción consecuencia de la interpelación sustanciada en esta cámara el pasado día dos de marzo me vinieron a la memoria las pedagógicas e ilustrativas comparecencias semestrales que el señor larrazabal la pasada legislatura en la comisión de instituciones para dar cuenta del grado de cumplimiento de las pnl aprobadas por este parlamento y recordaba

que aun aprobadas por la mayoría de la cámara no se podían llevar a cabo por distintos impedimentos hablaba de motivos legales si la propuesta realizada incurría en algún tipo de ilegalidad hablaba de motivos técnicos si lo planteado no se podía realizar por dichas circunstancia la

incluso hablaba de motivos de oportunidad y finalmente que es donde yo inicialmente ubicaba su propuesta

cuando se daban varias de estas circunstancias la señora consejera en su respuesta el día dos de marzo

y las incidencias que habían surgido que hacían imposible al menos desde todo parámetro del rigor y la seriedad que debe regir la política en este tipo de inversiones

el proyecto constructivo del tramo de moyua rekalde por tanto los problemas de tipo técnico que antes mencionaba y además su propuesta no se correspondía al menos cuantitativamente como se ha mencionado con su enmienda presupuestaria número ochenta a los presupuestos de este ejercicio

para dar impulso a las nuevas líneas de metro bilbao no sería posible dicha licitación por tanto problemas de tipo económico decía antes que su enmienda lo que hace es poner en la agenda del gobierno vasco esta materia bueno yo le digo que a pesar de su enmienda

en su programa de gobierno que es lo que guía la gestión de este gobierno pero dicho esto dicho esto a renglón seguido también he de reconocerle su actitud posibilista en este tema y la predisposición que ha mostrado para llegar a un acuerdo factible

y es de agradecer esta actitud por ello en la enmienda transaccional que le ofrecíamos y que hemos firmado el resto de grupos parlamentarios enmendantes instábamos al gobierno vasco

el estudio informativo de la línea cuatro garantizando un proceso participativo que se deberá canalizar obviamente en el oportuno trámite de información pública atendiendo así también a la enmienda de adicción planteada por eh bildu y en segundo lugar

para licitar el proyecto constructivo moyua rekalde por tanto como ve compromisos presupuesto del dos mil dieciocho

compromiso también hay que hacer poner en valor cuáles son los compromisos y los hechos que usted dice

otro de los compromisos de este gobierno para la presente legislatura y que también se lo ofrecíamos porque en esa línea enmendó el grupo popular a los presupuestos

necesarios para dotar de fondos a las obras del cierre del anillo tranviario

porque además de estar en el programa de gobierno como luego mencionaremos cuando hablamos de la línea cuatro del metro de bilbao no debemos considerarla

de un sistema integrado de transporte entendemos que el conjunto de los sistemas de transporte debe funcionar de forma integrada coordinada y sin duplicidades nuestra apuesta es por la integración de los sistemas de transporte buscando que los recursos económicos materiales y humanos destinados al transporte sean eficientes

y ver como también se decía las disponibilidades económicas y presupuestarias pues bien decía usted a incidir que estos proyectos no llegan que los programas electorales están

aparece la línea cuatro del metro por tanto yo entiendo que es un poco contradicción si aparece en el programa de gobierno el que no sea una prioridad

el de la pasada legislatura decía avanzar en el desarrollo de los sistemas de transporte de ferrocarril metropolitano y tranviario en las capitales y su entorno de influencia y en esta línea la pasada legislatura y este programa de gobierno de la presente legislatura se establece el compromiso de prolongar el tranvía de bilbao para avanzar en el objetivo de completar el anillo tranviario

se cumplió precisamente su primer aniversario y continuar con los estudios de la línea cuatro y cinco usted cree que si están

otros dos habrá elecciones y la gente es bastante responsable e inteligente con estas materias y qué se ha hecho bueno pues aquí no les voy a aburrir repitiendo todos los detalles que facilitó la señora tapia

en ningún caso ha estado parada únicamente destacar como hecho relevante para lo acordado la imposibilidad que decíamos antes que en el desarrollo actual del proyecto constructivo

se hace un planteamiento constructivo absolutamente diferente del que existía en el estudio informativo del dos mil doce y ello hace que sea necesario reformular dicho estudio informativo porque no sirve para esa nueva solución como bien saben ustedes el estudio informativo del proyecto constructivo es el paso previo al proyecto constructivo

y como le manifestó también la consejera y aunque lo repita creo que es interesante y

y creo que la consejera le dijo que además de la línea cuatro se está trabajando en los estudios y proyectos de la línea cinco

en la llegada de la alta velocidad a bilbao en la construcción de la variante sur ferroviaria en la solución de conexión de metro bilbao con el campus de leioa y en la construcción de la variante ferroviaria de ermua por tanto como ve muchos proyectos

también con gipuzkoa y araba que requieren reflexión y que hay que analizar cada uno de los proyectos y evaluar lo que se denomina coste beneficio

de gobierno y diputación entre tanto se ha constituido la autoridad de la movilidad

cuya función principal es analizar entre todos entre las instituciones afectadas cómo se encuentra el transporte en el conjunto del territorio analizar cuáles son las necesidades a futuro

a las necesidades de la ciudadanía para dar un buen servicio usted entiende que esto es retrasar yo creo que esto es avanzar avanzar cualitativamente

dos mil dieciocho dos mil veintiocho que además de obtener la fotografía más actual determinase cuáles deben ser las líneas maestras de las instituciones durante los próximos años este trabajo estará realizado para el mes de julio de este año por tanto no llegue a conclusiones

la política de inversiones en infraestructuras hay que realizarla planificando bien reflexionando

pasamos la vida reflexionando preferimos que se nos achaque ser excesivamente reflexivos que reflexivos realizando ese análisis coste beneficio y preparando todos los proyectos para que en el momento necesario pueda llevarse a cabo y no haya que empezar a realizarlos por tanto una vez finalizada esta planificación y realizado el análisis coste beneficio

las decisiones oportunas decisiones que se tomaran como digo entre todas las instituciones implicadas ayuntamiento diputación y gobierno con todos los proyectos finalizados y con todas la seriedad y el rigor del mundo no tenga duda de ello señora llanos se lo decía a la consejera se va a intentar

respondiendo a las necesidades que hay con la mejor de las soluciones en cada caso se va a hacer el trabajo correspondiente estudios informativos se está haciendo proyectos constructivos

el beneficio que se va a obtener y cuál es la mejor solución resulta imprescindible en esta situación y en toda racionalizar y priorizar los recursos públicos

somos los competentes para decidir en esta materia serán lógicamente las instituciones afectadas

respecto a lo que ha manifestado nos da lecciones en cuanto a escuchar a la ciudadanía

los jueces y fiscales antes hemos hablado sí escuchan a la ciudadanía para poner la prisión permanente la cadena permanente la cadena perpetua revisables en eso sí dice que nunca llegan incumpliendo de plazos bueno no tengo tiempo pero luego le hablaré si quiere del tav del intercambiador de urbinaga lo que sí me pareció injusto e incierto es decir

son una prioridad para este gobierno creo que se demuestra día a día

que se lo deje sujeto a interpretación y lo último que ha dicho que el compromiso que no cuesta nada aceptar

los compromisos de una manera muy ligera nosotros vemos desde un punto de vista de seriedad y responsabilidad y este compromiso pues es un compromiso

y es un compromiso y por tanto que se valore no que se diga que no cuesta nada

mozioarekin bat gatozelako eta uste genuelako aurrerapauso bat izan zitekeela es verdad que vamos a respaldar también el acuerdo al que se ha llegado por los grupos enmendantes a pesar de que como se ha dicho ya por algunas de las portavoces sigue siendo insuficiente pero es un paso

dos mil dieciocho esperamos que este estudio sea de una vez el definitivo

se han encargado para esta línea y que ese proyecto constructivo tenga suficiente reflejo presupuestario en los presupuestos del gobierno vasco del año que viene y a nuestro grupo elkarrekin podemos se introdujo una enmienda por valor de uno coma cuatro millónes de euros en la propuesta presupuestaria

ahí estaba también el compromiso de nuestro grupo con la línea cuatro baina gai honen historia ez da berria zoritxarrez eta uste dut merezi duela

merezi duela y además he escogido las palabras de una persona que representa a uno de los

del ayuntamiento de bilbao en el pleno del ayuntamiento relataba lo que ha sido

de demagogia veintidos de septiembre del dos mil ocho se adjudicó el estudio básico a la ingeniería justo un año después el veintidós de septiembre dos mil nueve se presenta ese estudio

ese mismo año se decidió conectar la línea tres con la línea cuatro del metro de bilbao en dos mil once finalizó el estudio informativo en dos mil doce se da el visto bueno y definitivo al estudio informativo por el consorcio en transportes de bizkaia y se termina uno de los primero cálculos del coste de la línea que serían trescientos ochenta millónes

variando el día dieciséis de diciembre de dos mil quince se acuerda licitar el proyecto constructivo y el día veinte de octubre del año dieciséis se adjudica a sener ese proyecto que estamos esperando en estos momento mientras tiempo ahí ha habido discursos contradictorios de muchas de las personas que han ostentado las responsabilidades

ha relatado la señora llanos vamos que llevamos diez años diez para unos estudios

constructivo ya no para poner en marcha una línea tampoco para poner en marcha la obra sino para estudios y el proyecto constructivo

el ayuntamiento de bilbao iniciativas similares fueron rechazadas veremos lo que pasa la semana que viene en las juntas generales

pero yo creo que suave suave lo que queramos pero recuerdo aquel lema

recuerda mucho a ese lema de euskadi un país en marcha pero que creo que con la línea cuatro es un país en marcha muy

lenta porque después del acuerdo de hoy yo creo que en breve el gobierno vasco debería comprometerse también a poner unos plazos al comienzo

transaccionada de hoy no se ha concretado al menos si hay voluntad política como parece que la hay en el acuerdo de hoy

en irala y conozco muy bien esas promesas tanto del ayuntamiento como de otras instituciones que van y vienen esas promesas que el año electoral y los meses antes empiezan a anunciar

muy leídos en bizkaia y creo que ya todo el mundo sabe a quién me estoy refiriendo como si fueran en bucle la línea cuatro de bilbao yo creo que todo el mundo coincide que es la única solución viable para el sur de bilbao ha habido otras como es la del tranvía de rekalde una solución que bueno se demostró fallida o no pudo llevarse adelante pero creo que hay consenso entre todos los grupos para conectar

que además es una línea que evidentemente y efectivamente es una línea que va a ser cara como todas las líneas del metro de bilbao pero que es necesaria estamos hablando de conectar

que son por de pronto los que viven y las que viven en los barrios de irala rekalde

etcétera yo creo que además conectar con el que

bilbao de la mayor concentración de población que tenemos en nuestro país y yo creo que si apostamos por esa movilidad sostenible y coincidimos al menos

de movilidad otra cosa habría que analizar las propuestas concretas de ir sacando también el vehículo privado de las calles de bilbao y apostar por la movilidad sostenible y yo creo que la línea cuatro de bilbao es fundamental para ir avanzando

hacia esa mayor movilidad porque además no solo es una cuestión

determina muchas cosas y determina el día a día de las personas determina el acceso a los servicios públicos entre otros por ejemplo podéis o pueden preguntar en irala lo que cuesta llegar al hospital de basurto que está a escasos diez minutos cinco minutos en coche y lo que cuesta llegar en autobús que hay un autobús

porque muchas veces cuando hablamos de infraestructuras y curiosamente yo no soy el portavoz en esta materia

de bilbao pero detrás de todo eso hay personas personas que tienen el mismo derecho que el resto a tener unos servicios públicos de calidad a tener una vida

el día a día porque los servicios públicos los transportes públicos vertebran el territorio vertebran el territorio y además contribuyen también al desarrollo económico de los barrios

diferente que tiene por ejemplo bilbao entre el centro y la periferia ayudan también al desarrollo económico y por tanto también a crear empleo

pero también he oído hablando de grandes proyectos al señor zorrilla hablando

parados o que van en una marcha lenta o que van con un desarrollo lento y

de leioa o de la conexión al parque tecnológico yo les invitaría aunque sea materia de las juntas generales de bizkaia a montarse en el autobús

encima de la barra de sujeción o comprobar las fotos que los trabajadores del parque tecnológico suben y las trabajadoras suben todos los lunes y martes por la mañana y todos los días de la semana de cómo van de saturados los

sitios volviendo a los barrios de

metroaren alde unas movilizaciones que no vienen de nuevo en el sur de bilbao porque todos

los han conseguido con sangre sudor y lágrimas y mucha movilización en la calle y como vecino además de irala tengo que reconocer también esa lucha histórica de la asociación como vecino que he sido de irala esa lucha histórica de la asociación de vecinos por la dignificación de las condiciones

en irala y también en otros barrios del sur muchas movilizaciones kukutzaren eraispenaren aurka mobilizatu ziren ere auzotarrek bilbo ebakitzen duen

izan dezaten borrokatu dute baita ere se han movilizado también por el soterramiento de las vías años y años de promesas incumplidas de retrasos

mientras veían que obras que empezaban más tarde en el centro de bilbao acababan antes

y eso los que hemos vivido y la gente que conoce estos barrios lo siente así

moverse de esos barrios sino que quiere cohesionarlos que quiere mejor y mayores servicios públicos para esos barrios y que a pesar de la dejadez institucional histórica han mantenido los barrios de pie y yo creo que este momento y que este acuerdo

a cumplir espero que este acuerdo sea el principio del fin de esa dejadez histórica de las instituciones para con el sur de bilbao eskerrik asko

es verdad que lo iba a hacer desde el sitio lo que pasa que me cuesta más mirar

quiero empezar por lo que creo que es lo más importante que es por la consecución del acuerdo en primer lugar dar las gracias a la señora ugarte al señor andueza y al señor zorrilla por la firma de y al señor martínez por el apoyo la verdad es que suscribo muchas

no se trataba de ser ácida en mi intervención pero sí se trataba de hacer una cronología

de lo que ha sido la línea de las dificultades que ha tenido y hablaba se hablaba aquí por parte de la señora ugarte de la rentabilidad social de las infraestructuras y de lo caro que puede ser una infraestructura evidentemente una infraestructura como una línea de metro

pero desde luego si se pone en relación costo con rentabilidad social con lo que supone para los vecinos de rekalde en ganar en calidad de vida en poder comunicarse como he dicho antes con el resto de bilbao

ese coste pues es infinitamente más reducido y hablaba

la línea cuatro y nosotros lo hemos traído aquí en muchas ocasiones la perseverancia es de los vecinos de los vecinos y cuando decía

estaban olvidados lo dicen ellos nosotros nos hemos reunido en muchas ocasiones con los vecinos y siempre nos han puesto de manifiesto que se sienten absolutamente olvidados

prioridades del gobierno vasco y yo fundamentalmente como decía hoy lo que quiero aquí es poner en valor el acuerdo lo que parecía imposible lo que parecía imposible

lo que no existía un compromiso porque no existía no existían los presupuestos por eso metimos

puede aparecer en el programa de gobierno también aparecía en la legislatura pasada y pasó prácticamente en blanco

todos porque ese compromiso existe porque lo que parecía imposible ahora es posible y porque los que ganan fundamentalmente son los vecinos de rekalde por eso

por poder llegar a este acuerdo que es a nuestro juicio un primer paso un paso pequeño pero creo que para los vecinos supone un gran paso porque supone un compromiso de las instituciones con ellos

los que con su pelea los que con su lucha han conseguido que este pequeño paso haya sido posible dar que en otras instituciones no ha sido posible y

hoy sin embargo esa imposibilidad se ha transformado en posibilidad muchas gracias

esa línea y creo que los datos están ahí los hechos están ahí los he expuesto y creo que absolutamente nadie puede negarlo pero es cierto y también lo he dicho en mi primera intervención que muchas veces la disponibilidad presupuestaria habida cuenta las circunstancias económicas no es la que todos desearíamos

hubiera sido muchísimo mayor espero y deseo

para que este proyecto se materialice lo antes posible yo qué quiere que le diga a mí me gustaría que este proyecto cogiera velocidad de tren de alta velocidad y no del tren

que es un paso fundamental creo que es un paso determinante y creo que es mucho más determinante que todos los grupos parlamentarios que estamos representados en esta cámara hoy hayamos expresado

hecho realidad a mí tampoco me cabe ninguna duda que a la señora tapia a la señora consejera también le encantaría darle un impulso pero yo entiendo que no es marca de este gobierno ir haciendo promesas que luego no se puedan cumplir a la señora tapia probablemente le gustaría cumplir con promesas como las que hace el señor ministro de fomento que va prometiendo llegadas del ave a todas las cabeceras de comarca

creo que tenemos que ser bastante más racionales ir paso a paso como decía ser consciente de la realidad que tenemos y sobre todo apostar de verdad por los proyectos para que realmente

nire eserlekutik labur labur bakarrik erantzuteko elkarrekin podemos taldeari decía el señor martínez que es insuficiente el acuerdo logrado hasta hoy yo le quiero recordar unas palabras muy conocidas y repetidas del señor areso ejerciendo de alcalde de bilbao que los elefantes se comen a cachitos

por supuesto habla de otros proyectos por supuesto que habrá más proyectos no tenga ninguna duda que la autoridad de la movilidad de bizkaia planteará nuevos proyectos porque estamos ante un país vivo y en tercer lugar respecto a los plazos dice de establecer plazos bueno pues le hemos dicho que para julio de este año

donde las instituciones implicadas determinarán las prioridades y esos plazos que usted demandaba besterik gabe eskerrik asko